yo creo que el debate tendríamos que centrarlo un poco cuando digo centrarlo un poco

se confunde lo que es un banco y su gestión y se confunde lo que son

parto de la base que de forma intencionada no entiendo que en este tema se le inste al gobierno vasco para algo porque el gobierno vasco poco o nada pinta

por lo tanto poco o nada puede hacer no estamos en un proceso de liquidación de las cajas como se plantea en la proposición

en la transformación de las cajas en fundaciones tal y como exige la ley

y aquí nos tenemos que hacer una pregunta es decir cuando una ley dice que durante este año se tienen que transformar las cajas en fundaciones

usted no lo hace o las cajas no lo hacen se lo harán otros pues parece que esa es la postura que bildu viene a plantear aquí

las articulen y las nombren otros en vez de las propias cajas de ahorro es una opción a nosotros no nos parece

las que lideren su proceso de transformación en fundaciones que al final la diferencia entre caja y fundación de naturaleza jurídica pues si el representante de bildu me la quiere explicar a mi yo estaré muy atento a entender exactamente cuál es la diferencia entre una cosa y otra a efectos de naturaleza jurídica

nadie ha sido capaz de decir cuál es exactamente la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros porque evidentemente no son sociedades evidentemente no son fundaciones y evidentemente no son asociaciones pero bueno como estaban en ese limbo jurídico pues parece que van a dejar de estarlo

que más da que se llamen fundaciones o cajas si el sistema de funcionamiento es el mismo ahora por qué bildu prefiere que esas fundaciones las nombre

sino otros organismos reguladores que son lo que prevé la ley nosotros no lo entendemos sobre todo alguien que está hablando todo el día del derecho a decidir y del derecho

lo que ellos quieren parece que ustedes lo que prefieren o quieren es que sean otros los que hagan esa transformación nosotros no lo entendemos y no estamos de acuerdo

su propuesta es suspender el proceso de privatización de las cajas de ahorro

porque en europa prohibían ni siquiera que parecieran públicas

fundadoras a menos del cincuenta por ciento para que las cajas dejaran de ser públicas pudieran ser privadas y digo antes de las fusiones y de los bancos

en la unión europea en esa unión europea que ustedes ayer en la ponencia de autogobierno decían que estaban muy de acuerdo en querer estar pero luego no quieren cumplir ninguna de las normas que tiene al parecer

esto se hizo hace ya muchos años hace muchos años y hasta donde yo recuerdo

hace más de quince años pues no entiendo a que viene esto de

no tiene no hay mayoría las instituciones públicas porque lo prohibía la normativa europea

que no queremos que las cajas futuras fundaciones no vendan las acciones que tengan de kutxabank pero las acciones de kutxabank no sé ustedes qué es lo que pretenden que kutxabank no pueda vendar las acciones de iberdrola por ejemplo que tienen porque es lo único que puedo entender en lo que ustedes nos han planteado pues a lo mejor a kutxabank le interesa algún día vender las acciones que tiene de

no sé porque no va a poder hacerlo si es bueno para el banco y para los accionistas que recuerdo que la obra social que por cierto

la obra social brilla por su ausencia por eso digo que habría que centrar aquí un poco el tema de lo que se está planteando

porque luego nos dicen que se refuerce el carácter social y público de las cajas vascas kutxabank mediante acuerdos políticos y legislativos

usted lo sabe y por eso las cajas tuvieron que transformarse por lo tanto

que las cajas y kutxabank dejen de operar como entidad bancaria

de su propuesta porque aquí sí empezamos a entender porque ustedes lo que nos están diciendo es que lo que quieren es que se articule un sistema financiero de cara a euskal herria para impulsar el tejido productivo de nuestro país bueno bien ahora ya nos empezamos a entender pero supongo que es fuera de la unión europea

si ustedes quieren planear un sistema financiero al margen de la normativa de la unión europea dígannos

y luego nos explican esto de la socialización efectiva del crédito y del ahorro o sea

que el dinero que tienen los impositores en kutxabank se lo van a quitar lo van a socializar digo para que todo el mundo lo tengamos claro

saque sus ahorros de kutxabank para que se vaya a otros sitios donde no le socialicen los ahorros eso es lo que están planteando aquí

nosotros no estamos de acuerdo muchas gracias eskerrik asko

porque evidentemente no es un asunto menor y me parece que el parlamento es un buen marco para hacer algunas reflexiones sobre algo que está en este momento

y que tiene trascendencia tiene importancia para el país vasco tiene importancia para los ciudadanos en los próximos años yo voy a entrar al fondo del asunto pero antes quisiera hacer a modo de introducción cuatro referencias a cosas que me parece que son también importantes señalar

que parece que ya ni tan siquiera existe la historia y por lo tanto sería bueno dejar algunas cosas bien claras la primera de ellas es que las cajas

hunden sus raíces en el caso de la decana que sería la caja vital

y las otras dos son centenarias por lo tanto estamos hablando de unos instrumentos de carácter financiero de carácter económico de carácter social

a muchísimos años y que es una demostración de que han sido útiles y que ha sido un recurso para

economía y para hacer sociedad absolutamente válido algo que ahora se pretende denostar y todo parece que lo que hay sobre las cajas es solamente manchones negros y que siempre han estado en un estadio de manipulación por parte de la política

de perversión y como esto es absolutamente injusto era la primera

la segunda es que siempre las cajas han estado dirigidas por profesionales es mentira que hayan estado dirigidas por políticos por lo menos en lo que se refiere

de las entidades financieras pero ahí ha habido profesionales profesionales algunos con muchísimo mérito a lo largo de muchísimo tiempo que igual sería bueno que alzaran la voz y que se dejaran ver

las entidades financieras yo como tercera referencia diré una y es que

hubo un informe profesional por el cual se alertó de esa burbuja inmobiliaria y

que durante años probablemente se perdería mucho dinero porque se podía especular y ganar y que algunos nos llamarían tontos pero que al que le pillara le iba a pillar probablemente con las manos en la masa

muy precaria esto es algo que ha ocurrido en otras cajas no ha ocurrido en el país vasco y desde luego no ocurrió en caja vital porque había esa visión desde los profesionales

más allá de que muchos quisieran mirar hacia otro lado por lo tanto también esto está en el ámbito de la política porque fueron representantes profesionales los que plantearon aquello

decidimos que efectivamente era un riesgo del que había que salirse

en este último tiempo en el que estamos viviendo yo lo que conozco y supongo que todos los demás porque así se nos ha hecho llegar es que la banca privada en estados unidos en irlanda en islandia en reino unido en alemania en francia en bélgica en holanda

la banca privada la banca dirigida gobernada exclusivamente por profesionales

a bancos importantísimos que han tenido que ser algunos de ellos rescatados con el dinero público como también ha ocurrido en nuestro país por lo tanto

que son falsos que intentan solamente echar más porquería sobre la política y que yo desde luego

he querido hacer esta introducción aquí entrando en el asunto de fondo que se nos plantea es cierto que desde el año dos mil once hay un proceso

de privatización esto es evidente discutir si esto es privatización o no es que es

efectivamente estamos en un proceso de privatización un proceso de privatización porque ha habido sucesivas modificaciones legislativas efectivamente la última de ellas que hoy nos ocupa es una modificación legislativa que estuvo pactada con el partido nacionalista vasco y con el partido popular en cortes generales esto es así pero efectivamente estamos sometidos también a lo que esas leyes establecen y a cuál es la acción de la política sobre esas leyes si tenemos algo que decir o no tenemos nada que decir si tenemos algo que hacer o no tenemos algo que hacer por lo tanto efectivamente en este momento con estas modificaciones legislativas a las cajas vascas se les plantea una disyuntiva que es no hacer nada que es lo que usted propone o igual usted no propone exactamente no hacer nada usted propone

la situación política pongamos una bandera de soberanía alrededor de las cajas vascas y a esperar si vienen ya veremos cómo les contestamos bueno probablemente eso en esa política ofensiva defensiva de bildu puede tener sentido nos quieren mete mano nos quieren privatizar nos quieren nos quieren nos quieren y entonces el invasor

de la invasión pues probablemente su posición tiene sentido en una dialéctica política de decir cuál es el aporte

en el país vasco es decir qué hacen las cajas en el tejido productivo qué hacen las cajas en el tejido social qué hacen como obra social qué hacen como agentes de instrumentalización del crédito tanto para lo público como para lo privado como las personas si nosotros lo único que hacemos es exhibir una bandera probablemente estaríamos acompañándoles en un ejercicio solemne de irresponsabilidad y esto es lo que obviamente nosotros no queremos hacer por lo tanto

o adaptarse a la ley y hablar en los márgenes de esa ley evidentemente en los márgenes de la ley hay todavía riesgos e incertidumbres en estos momentos se sabe que hay que ir

ni en qué cuantía se tiene que hacer ni cuál será

tiene que acudir efectivamente existe un riesgo que es en el futuro qué recursos se destinarán a la obra social esto no está escrito en ningún sitio

social podrá haber más política social en el país vasco o podrá haber menos política social en el país vasco y

tiene que entrar y nosotros queremos entrar en estos momentos claro que está en juego

de las cajas vascas en el diseño de la política y de la economía vasca y nosotros también queremos entrar

participado por la política y por tanto a través de la política por la ciudadanía o podemos dejar que el órgano regulador que el órgano de control que el banco de españa que quien corresponda sea quien por nuestra incapacidad para trabajar en los márgenes de la ley vaya determinando y decidiendo todo lo que hay que hacer con el futuro de las cajas

a esa situación nosotros tenemos un principio de acuerdo con el partido nacionalista vasco un principio de acuerdo que intenta poner unas bases para abordar ese tipo de cosas que todavía hoy

los socialistas efectivamente queremos que haya una participación política una participación la máxima posible participación política en las tres cajas claro que queremos eso y por eso queremos estar bien posicionados con las exigencias de la ley y con las limitaciones de la ley para que

de lo público porque efectivamente si hay peso de lo público podremos tener una economía

significa los socialistas tenemos muy claro y queremos la máxima obra social

lo que hoy sigue existiendo en las cajas nosotros queremos que fluya el crédito

a las personas a las empresas al tejido económico al tejido productivo

tenemos que tener una adaptación propia tenemos que tener el control no podemos dejarlo a que otros a que terceros a que ajenos al país vasco a que ajenos a las instituciones políticas del país vasco y de la representación de la ciudadanía sean los que vayan definiendo y decidiendo qué es lo que hay que hacer con las tres cajas

hay una ofensiva de privatización de las cajas las cajas han llegado a controlar o a operar con el cincuenta por ciento de los recursos del país vasco

era el instrumento financiero y de carácter económico más potente que había en el territorio y esto ha sido siempre

quienes solamente ven la economía desde una perspectiva privada

desde una perspectiva de lucro efectivamente ese es el peligro y ese el riesgo que permanentemente ha estado sobre las cajas y en estos momentos donde especulación de la política y de la economía se ha abierto desgraciadamente demasiado paso en nuestras vidas están dando pasos efectivamente no dan todos los pasos que les gustaría pero dan algunos claro que nos tenemos que posicionar frente a eso nosotros no queremos que siga avanzando la privatización de este segmente

composición social no queremos que avance pero para que no avance tenemos que dar un paso al frente y tenemos que decir cómo interpretamos la ley cómo la encaramos

que la ley no obliga a hacer una determinada privatización la ley lo que hace es poner una serie de filtros y de controles para que si no haces

todo sea más difícil tengas que dar más dotaciones tengas más dificultades para hacer inversiones tengas que hacer más planes financieros es decir tengas que hacer más elementos de control para que tengas menos recursos para que esté

permanentemente tutelada la acción de esas cajas

frente a otros segmentos financieros sea imposible es decir

es cierto que la ley plantea dos cosas si no entras en los márgenes de esta privatización

y por asfixia irás cada vez a menos nosotros pretendemos

y seguir manteniendo ese control público y social de las cajas vascas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

bertan esaten dugu manifiestan las cajas su firme intención de mantener la propiedad del cien por ciento de las acciones de la sociedad central

salvo que la operación viniera exigida por cualquier normativa aplicable o por un organismo de administración competente hau gure konpromisoa izan da orain

presidenta nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa original lo cierto es que tal como se ha explicado aquí no hay nada de lo que plantea eh bildu que pueda hacerse o incluso en algún caso

que ciertamente carecen de sentido y por lo tanto votaremos en contra

ya han explicado pues cada uno de los puntos que propone eh bildu y su carente sentido de toda lógica de lo que se propone

totalidad una planteada por el grupo popular y otra planteada firmada por el grupo nacionalistas vascos y por el grupo socialista

pueden tener sentido y que por lo tanto podían ser enmiendas que

en relación a esta cuestión sí que podemos decir que lo que se plantea ahí pues tiene cierta lógica tiene toda la lógica

cuál es la legalidad vigente que hay que aplicar también en euskadi lo cierto es que muchas de estas cuestiones ya las hemos tratado en otras ocasiones eh bildu ha venido planteando en diversas ocasiones iniciativas parlamentarias relacionadas con kutxabank hubo una iniciativa parlamentaria que pretendía asegurar el vínculo de kutxabank con su territorio hubo otro iniciativa parlamentaria de eh bildu para el mantenimiento y el fortalecimiento de la obra social de kutxabank

que hacía un mix de esas propuestas anteriores para garantizar que kutxabank sea un instrumento financiero que desarrolle determinadas políticas públicas para garantizar la obra social o para obstaculizar el proceso de privatización

insiste en la cuestión pero con una serie de propuestas que ciertamente carecen de sentido puestos a hacer historia cabe recordar también el hundimiento de las cajas de ahorros de muchas de ellas al menos

pero sí que cabe recordar el hundimiento de las cajas de ahorros consecuencia de su politización de su utilización por parte de los partidos políticos para beneficiar

y ancho del país esto ha ocurrido en los últimos años noes un mito es una realidad y lo cierto es que

el partido popular y ahí dentro estaba el partido socialista y ahí dentro estaba izquierda unida y también los sindicatos y esta politización

español el posterior rescate bancario y en fin dramas sociales que perjudicaron a miles y a miles de ciudadanos esto no es un mito esto es una realidad los responsables de la quiebra de ungran número de cajas de ahorros

fueron los partidos políticos que ocuparon y privatizaron las cajas de ahorros para ponerlas a su servicio lo que realmente llevó a su quiebra esto no tiene nada que ver con el control público garantizar el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos fue una privatización en el sentido de que los partidos políticos utilizaron las cajas de ahorros para beneficiarse a sí mismo una especie de

no es un mito es una realidad las cajas de ahorros politizadas contribuyeron a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria

absolutamente disparatados concedieron créditos arriesgados a empresarios afines al poder político y condonaron deudas a los partidos políticos y además emitieron las preferentes por ello nosotros

defendimos la despolitización de las cajas de ahorros y su profesionalización

casi siempre en solitario lo defendimos también en este parlamento en varias ocasiones y lo defendimos también en este parlamento cuando se debatió se votó y se aprobó la actual ley de cajas ciertamente las cajas vascas

esto es cierto pero era y es indispensable acabar con el riesgo de su politización y ciertamente en los últimos tiempos desde europa se nos ha ido

y se nos obliga a profesionalizar la gestión de las entidades financieras por lo tanto tenemos una legalidad europea una legalidad española

día uno de enero del año dos mil doce sabemos que bbk kutxa y vital trasladaron su negocio financiero a kutxabank y son las únicas accionistas del nuevo banco

la obra social estas cajas de ahorros se financian de los beneficios de kutxabank y su principal cometido es gestionar

y se fortalezca la obra social y que por lo tanto a kutxabank le vaya bien para que bbk kutxa y vital puedan desarrollar más

la ley de cajas y fundaciones bancarias aprobado a finales del año dos mil trece nosotros en fin presentamos nuestras propias enmiendas

porque pensábamos que no profundizaba en la necesaria

un hecho y es correcto que sea así que esta ley obliga a las cajas vascas a convertirse en fundaciones bancarias y a transferir su negocio financiero a un banco

y qué puede pasar a partir de ahora pues evidentemente lo que debe hacerse es cumplir la ley debemos cumplir la ley las cajas vascas deben transferir su negocio financiero

cosa que ya está hecha las cajas vascas deben convertirse en fundaciones bancarias y lo harán en las próximas fechas no hay por lo tanto alternativa a esto

en beneficio del conjunto de los ciudadanos sería interesante obviamente poder contar con una entidad financiera de primer nivel sería interesante garantizar una actuación profesional una gestión profesional en las fundaciones bancarias que obviamente deberán diversificar sus inversiones

su obra social para lo que deberá tener más recursos es fundamental que kutxabank pueda ser un banco fuerte y competitivo para lo que deberá ganar que sea gestionado de manera profesional que obtenga más beneficios y que como consecuencia de ello efectivamente se pueda destinar más dinero

social y para nosotros es algo absolutamente fundamental prioritario

que los partidos políticos dejen de manosear la cuestión esto a nosotros nos parece absolutamente fundamental y lo cierto es que los últimos tiempos en los últimos meses

por parte de la práctica totalidad de los partidos políticos que quieren condicionar el futuro de las fundaciones bancarias que quieren condicionar las decisiones que deba tomar en el futuro kutxabank y para nosotros es fundamental este asunto lograr la profesionalización cierta de kutxabank una gestión realmente profesional que obtenga los mejores beneficios que a partir de ahí se pueda destinar más dinero a obra social y todo esto en nuestra opinión sería beneficioso para el conjunto
de los ciudadanos vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta yo la verdad es que cada vez entiendo menos a algunos de izquierdas

de izquierdas o sea no entiendo que upyd nos diga esto de la politización de las cajas o de las fundaciones o como viene a ser cuando en fin hasta donde yo sé y recuerdo lo crearon

organismos públicos entonces no entiendo que siendo tan de izquierdas se nos diga que es que en fin no tiene que ver ningún tipo de control público

en estos organismos y por lo tanto pues no voy a entrar más en esa historia

y luego de repente vienen aquí a decirnos que está todo muy bien como está y que no hay que tocarlo

las cajas y kutxabank estén como están y hoy vienen a decirnos que tienen que seguir así como están que están muy bien pues así como están y nos viene a decir ahora que retira la propuesta que tienen claro no reconoce que es una barbaridad lo que han planteado nos dice que estudiemos

es que la fórmula que existe es la de las fundaciones es que ya viene marcado en la ley es que este debate es viejo

en las reformas de las leyes en europa en el congreso aquí es que ustedes pretenden reiniciar continuamente los debates

que es lo que ustedes a veces no se enteran o no quieren ver y luego

pero si ustedes la obra social en su iniciativa y en su planteamiento les da absolutamente igual

las fundaciones cajas como queramos llamarlos no tienen que vender nunca ninguna acción del banco o

la obra social se financia con los beneficios de ese banco oiga y si ese banco da pérdidas la obra social

cero no a poner vendemos la obra social para financiar las pérdidas del banco ese es su planteamiento

y luego encima nos viene a decir cómo tiene que ser el banco nos hacen la carta a los reyes magos le falta decir

pero yo hay una cosa que no les entiendo a ustedes y no les entiendo porque yo vengo asistiendo atónito verá yo no soy nacionalista digo

pero vengo asistiendo atónito desde hace un mes a una campaña

bildu y los sindicatos nacionalistas contra un banco que se llama kutxabank yo no sé si ustedes saben que

lo que más vale de un banco es la confianza de la gente en la calle y

a cómo la izquierda abertzale y los sindicatos abertzales

poniendo a parir literalmente al banco público vasco o lo que ustedes quieren que sea el banco público vasco y en su última propuesta

de lasocialización efectiva de crédito y del ahorro no podemos estar de acuerdo con el señor egibar cuando pregunta a ver si están planteando la expropiación

por lo tanto no aquí estamos hablando literalmente de nos quedamos con el dinero que tiene la gente en el banco entonces no puedo entender que desde un partido

tan nacionalista como la suya que supuestamente quieren un sistema financiero vasco lo que se dediquen es a poner a parir en fin

el banco más público y más vasco que en estos momentos existe

señora presidenta lo primero que quisiera saber es en qué momento del debate estamos porque no sé si estamos en un debate vacío si hay

retirada efectiva y por lo tanto ya no se va a seguir con el procedimiento o si hay opción aunque haya retirado la iniciativa una vez que se ha iniciado el debate de

si me lo explica eso me ayudaría a alguna cosa que igual después digo

erreplikan gaude estamos en la réplica y no se puede votar porque el proponente lo ha retirado pero estamos en la réplica porque todos una vez iniciado el turno

pues entonces dos cosas nada más una a upyd señor maneiro

porque he apreciado en su intervención una gran dosis de antipolítica y yo creo que lo debería de

yo creo que la única diferencia que existe entre una caja y un banco es que la caja sus beneficios los destina a una obra social y yo creo que la obra social

la historia de la obra social incluso de las cajas vascas y usted verá como hubo épocas donde se hacía beneficencia donde se hacia caridad donde se hacían cosas que con la función social

a las oportunidades a la justicia social yo creo que había poco que ver yo no sé si usted pretende que esto quede en manos de profesionales o si cree que precisamente la misión

es velar por esa justicia social y por esa función social por lo tanto cuando usted permanentemente está tratando de presentar a las cajas como lugares de alta contaminación por la presencia de la política yo creo que usted está haciendo la antipolítica y como me parece que

absolutamente fuera de lugar pues en fin yo le invito a que se lo piense un poquito

sobre los abusos o excesos que pueda cometer la política y otra cosa es que sobre eso se quiera denostar a la política se quiera orillar

social y de obra social las que resolverán los problemas del futuro en el país y en relación con bildu señor isasi yo no sé si lo suyo es falta de rigor es desorientación

porque claro esto no es nuevo esta es una iniciativa que usted trae aquí que ya la había traído que la estuvo posponiendo

la ha traído hasta ahora que durante este tiempo están corriendo plazos que sabe que hay que tomar iniciativas que además

un acuerdo hay un principio de acuerdo hay un trabajo que ya está haciéndose tanto en las cajas como entre los partidos políticos aquí a jugar con una cosa tan seria pues la verdad es que es

las cajas vascas da la impresión de que absolutamente nada yo creo que lo único que le importa es colocar su discurso es decir aquel que hace trampa que viene

para la ciudadanía y luego lo retira alegremente lo que está haciendo es una trampa al debate y una trampa a la agenda de la política y una trampa a las expectativas públicas de lo que produce este debate

de llevar a alguna reflexión porque si para usted el parlamento es un cachondeo pues muy bien entonces está haciéndolo bien pero si para usted el parlamento es un lugar

este es un tema muy serio y que las cajas vascas tengan un futuro o que tengan otro es un tema muy serio y que usted hoy hay tenido la oportunidad de presentar una alternativa

del rigor y de la responsabilidad que tiene su proyecto político por lo tanto

sucesivas ocasiones no estaría mal que sus actos tuvieran un mínimo de rigor un mínimo de seriedad y que dejaran

edo demagogia egiten da edo besteak mehatxatzen dira y mucho me temo que lo que se ha hecho hoy aquí primero propiciar un debate evitar la votación y reproducir

ha dicho es el previo es el antecedente de otras decisiones que van a suponer ojalá me equivoque

porque os entra vértigo cuando hay que tomar las decisiones

a calibrar y a valorar también las propuestas concretas como las que se han hecho

ha dicho que lleva quince días bildu sin responder

de kutxa del consejo de kutxa sindicatos incluidos para participar en ese grupo de trabajo y ahora se nos propone herri akordio bat

y voy a responder un poco al señor damborenea porque usted dice

contra una entidad como kutxabank desde una perspectiva nacionalista

y se ofuscan no con kutxabank se ofuscan con el pnv se aplica la política del todo vale y no importa tanto si se desprestigia a kutxabank como acusar al partido nacionalista vasco de tener intereses ocultos

querer favorecer a los amigos etcétera etcétera son diseños de revolucionarios de salón hay mucho revolucionario de salón

y que después se aplica la política y sucede lo que sucede porque hay propuestas concretas que ellos saben que ni se cuestiona

la posibilidad de mantener la propiedad del cien por ciento ellos también firmaron salvo imperativo legal o que algún organismo lo determinara

el momento de afrontar la decisión porque también hay responsabilidades personales en esos consejos de administración y que en vez de tomar las decisiones y asumir las responsabilidades se opta por

es lo que va a suceder está visto ez dauka sentidurik

sí gracias presidenta independientemente de que finalmente nos se vote este iniciativa obviamente yo quería responderle al señor txarli prieto cuando acusa a upyd

y al partido socialista y al partido popular que la antipolítica es haber arruinado a la mitad del sistema financiero español no hay mayor antipolítica que esta

de la mano de izquierda unida y de algunos sindicatos han logrado en españa durante los últimos años y esta es realmente la antipolítica que nosotros queremos desterrar esto es lo que nosotros queremos denunciar no hay mayor antipolítica que el fraude de las preferentes

no hay mayor antipolítica que tratar de condicionar las decisiones de las cajas de ahorros

en beneficio no de los ciudadanos sino en beneficio de determinados intereses de determinados partidos políticos y esto es lo que ustedes han hecho en españa durante los últimos tiempos más allá de que es cierto de que las cajas vascas han estado mejor gestionadas

antipolítica que tratar de colocar a los amigos de algunos en determinados consejos de administración no hay mayor antipolítica que el fraude político consistente en tratar de lograr ventajas políticas prebendas económicas y arruinar al país

a la mitad del país arruinar a miles y miles de ciudadanos con

en españa en los últimos tiempos esto es la antipolítica

no es plantear que las cajas de ahorros tuvieron que estar bien gestionadas que era fundamental que estuvieran bien gestionadas o pedir que las fundaciones bancarias

que las decisiones de los bancos se realicen en función de lo que los verdaderos técnicos en la materia deban llevar a cabo esto

no hay mayor antipolítica por lo tanto que el fraude que ustedes han cometido el manoseo político y la colonización política ya digo orquestada en los últimos años a lo largo y ancho de españa para beneficiar

amigos de determinados partidos políticos eso

no es la antipolítica eso es política en mayúsculas denunciar lo que algunos de ustedes algunos de sus partidos políticos han hecho en españa en los últimos tiempos

a la ruina llevar a la ruina a miles y miles de ciudadanos eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta señorías

quería dar unos datos que nos han hecho traer aquí esta proposición

su acción los violentos la iglesia de san josé de barakaldo acto firmado por ernai

también en barakaldo allí los que perpetran la acción señalan a una concejala del partido popular

señalan su domicilio y la acusan de chivata

los hechos que está contemplando en vivo jueves uno de mayo destrozos en comercios

más de treinta locales sufrieron daños cuarenta encapuchado siembran el pánico en el casco viejo de bilbao

solo semanas atrás algunos meses atrás podríamos hablar también de ataques a sedes de partidos políticos

la violencia se extiende a otros municipios encapuchados atacan bancos y comercios en diez localidades del país vasco pues bien

proposición de ley que hoy traemos aquí trata de compartir una preocupación

comienzan a repetirse de manera periódica en nuestra comunidad se trata de altercados públicos organizados ataques a comercios a entidades de ahorro contra el mobiliario público contra las sedes de partidos políticos

hechos que a nuestro juicio por su gravedad merecen ser denunciados y ser condenados por esta cámara ser condenados y denunciados por el parlamento vasco en el que los representantes de la ciudadanía

quienes representamos a la ciudadanía tenemos que saber construir juntos y trasladar de una manera clara al conjunto de la sociedad vasca

a los protagonistas de estos hechos que deslegitimen sus métodos profundamente antidemocráticos que desenmascare a quienes

de una algarada ocultan una estrategia organizada una estrategia organizada y tratan además de socializar un discurso antisistema

y de erosionar la convivencia justifican la violencia social de una manera permanente y sistemática y por eso nosotros

la responsabilidad de combatirles de combatir la intolerancia nuestra respuesta debe ser la defensa de la ley y

la respuesta de esta cámara de las instituciones públicas debe ser la respuesta de la ley la defensa del espacio público la defensa de los valores cívicos y de la convivencia debemos reclamar desde aquí a todos los poderes públicos diligencia a la hora de cumplir

debemos mantener también y por eso traemos nosotros este asunto aquí debemos mantener un apoyo decidido

debemos de trasladar desde aquí un apoyo decidido a las distintas policías

de todos aquellos que protegen cada día los derechos de todas las personas de quienes tienen el deber de proteger

el derecho a la seguridad en un

en un estado de derecho es algo muy valioso es algo muy preciado el derecho a la seguridad de las personas a la seguridad en el espacio público es algo que tenemos

es un derecho fundamental que debemos considerar básico en una sociedad

democrática en democracia no caben ni puede caber resquicios para la impunidad y lo que muchas veces se ha trasladado

a través de los medios de comunicación lo que va calando que aquí hay quienes tratan de campar a sus anchas con cierta impunidad esta sociedad ha pagado un precio muy alto ya yo creo que todos nosotros

de los errores y deberíamos aprender también de los aciertos de aquellas cosas que funcionan a la hora de combatir a los intolerantes pero quién está detrás

a los que me refería antes quién está detrás de muchos de estos hechos que yo me atrevería a calificar aquí de corte fascista que buscan la intimidación de las personas de manera abierta pública su señalamiento y que nos parecen absolutamente rechazables e incompatibles con los más elementales principios éticos y democráticos buenos pues en muchos de estos casos se encuentra firmando

quiénes son las juventudes de la extrema izquierda independentista vinculadas a sortu según los medios de comunicación

nos cuentan además que en algunas de sus protestas callejeras

aparecía en los medios de comunicación son los que firman los que graban

en nuestra opinión no hacerles frente hoy

a quienes tratan de alterar erosionar nuestra convivencia supone además de un enorme error además

falta de coraje cívico nosotros estamos seguros de que esta sociedad ya ha sufrido bastante para tener que seguir aguantando

en la construcción de nuestra convivencia de la convivencia social se trata desde aquí de buscar un acuerdo que permita a esta cámara que nos permita a todos exigir también de los poderes públicos una respuesta contundente clara democrática cívica

demuestran permanentemente con sus actos con sus actitudes su grado de intolerancia y su falta de respeto por la convivencia democrática en nuestra sociedad

nacionalista vasco en el que tratamos de recoger esa pretensión hemos coincidido también en el fondo en la necesidad de recoger

la preocupación la necesidad de dar una respuesta clara de prestar un apoyo a las fuerzas de seguridad que tienen la obligación de proteger

en defensa de nuestros valores de los valores cívicos de los valores democráticos en defensa de la convivencia y para trabajar también por una sociedad

probablemente no estemos ante un rebrote y así lo dicen lo ha dicho

que suponga una involución en el camino de la paz que comenzó en el año dos mil once

de eta pero desde luego no es como para que los partidos políticos como para que las instituciones principales de este país para que los responsables públicos

la persistencia de este tipo de actuaciones de este tipo de comportamientos

a años de tensiones y a años de violencia se mantengan una vez de que la mayoría política en este país

se mantengan y se justifiquen este tipo de acciones no es repito probablemente un rebrote de la kale borroka que anuncie

yo creo que hay motivos de preocupación y que exigen un pronunciamiento público de todos es sintomático que la organización juvenil de uno de los principales partidos de este país

es sintomático y no por lo positivo

que llegue a publicar un vídeo propio de factura propia

sino contra personas contra representantes políticos

creíamos que todos nos habíamos comprometido con las vías pacíficas y democráticas y con el respeto a la voluntad popular y a la representación y a las opiniones de todos los ciudadanos de todas las ciudadanas desde luego en todo caso lo que está claro es que

y la construcción de la convivencia democrática en euskadi ese es el anticamino y por eso es precisamente necesario un pronunciamiento

en contra de este tipo de acciones en contra de este tipo de comportamientos

todo tipo de expresión de violencia y más de violencia relacionada no voy a decir de motivación política pero relacionada con la política

es necesario construir una cultura de paz entre todos y por eso la enmienda de transacción que hemos firmado en la enmienda que nosotros presentábamos y en la

y aprovecho la ocasión para agradecer al señor oyarzabal la disposición a transar a acordar

que demos también en eso ejemplos de que somos capaces de encontrar

nos podamos poner de acuerdo en unos mínimos comunes y es que ese tipo de comportamientos ese tipo de acciones ese tipo de persecución a los responsables políticos están fuera de lugar en este país y es necesario y por eso traemos la propuesta una propuesta que creo que es abierta en el que podemos encontrarnos reflejados todos y sería

que podamos avanzar en esos acuerdos es importante avanzar en la construcción de espacios de encuentro espacios de encuentro que nos permitan a todos consolidar la paz y la convivencia en este país y construyamos una sociedad

que abandone para siempre expresiones de violencia

pasado y pretenden condicionar nuestro futuro por eso

nos adherimos a esta enmienda transaccional y para ella pido el voto unánime de la cámara nada más gracias

sí gracias presidenta obviamente pensábamos votar a favor de la iniciativa original nos parecía correcta y de ahí que no presentáramos ninguna enmienda de totalidad finalmente se ha firmado una transaccional que también nos parece correcta más allá de que

algún comentario en relación a algunas cosas de las que se dicen en esa transaccional que por otro lado ya digo que me parece correcta y que la apoyaremos

iniciativa que efectivamente vuelve a condenar la kale borroka y los actos de intimidación llevados a cabo por las organizaciones satélites de la izquierda

por ernai una formación que es claramente antidemocrática que es la organización juvenil

y que se está caracterizando por llevar a cabo acciones que son puro fascismo esto hay que decirlo así no solamente la acción concreta de atacar bienes o entidades financieras

de publicitar esas acciones

legítimas y pacíficas e incluso de defenderlas en e i te be cosa que también tuvimos ocasión de observar por lo tanto

nada que objetar a esta iniciativa todo lo contrario estamos de acuerdo con ella

lógicamente dos tipos de actuación la actuación fascista de una organización antidemocrática como ernai y la actuación

digna de elogio y de aplauso de una ciudadana en este caso una concejala del partido popular en barakaldo que al observar lo que está ocurriendo

de ciudadano que es llamar a la policía para avisar de los hechos nosotros evidentemente tuvimos también la ocasión de mostrar nuestra solidaridad

con ella que defendemos lo que hizo y que tiene todo nuestro apoyo porque su comportamiento fue absolutamente ejemplar dicho esto yo quiero denunciar

no lo ha dicho el señor oyarzabal tampoco lo ha dicho el señor iturrate pero lo cierto es que la actuación posterior de e i te be en relación a esta cuestión concreta de lo que ocurrió el día uno de mayo fue absolutamente vergonzosa

la ocasión de ver un video que está en las redes sociales y observar cuál es la actitud

de un programa concreto de e i te be que da voz en su programa a la portavoz de ernai para que explique con pelos y señales qué es lo que han hecho por qué lo han hecho y pueda expresar sus opiniones a esa cuestión a nosotros ciertamente nos pareció absolutamente lamentable cómo presenta esta periodista el video en cuestión lo califica como video polémico

le pregunta a la representante del partido popular si se ha puesto en contacto con la portavoz de ernai

para que le explique las razones por las cuales llevaron a cabo esa acción en ese programa de televisión entrevistan a la vez a la ciudadana

de una organización que ha llevado a cabo esa actuación fascista es ciertamente sorprendente entrevista a la portavoz de ernai y le sitúa en el mismo plano que a la víctima y ciertamente

de ese ente público la portavoz de ernai justifica la acción incluso acusa

de criminalizar esa acción por haber llamado a la policía y por no sumado a esa acción llevada a cabo por ernai cómo califica la portavoz de ernai estos hechos como un marcaje completamente legítimo contra kutxabank una acción pacífica y totalmente legítima

en ese programa de televisión mientras la concejala del partido popular allí presente escucha sorprendida lo que está escuchando cómo

voz a la representante de una organización antidemocrática que acaba de llevar a cabo un acto absolutamente fascista la periodista le dice a la portavoz de ernai en un momento de la entrevista en fin llamen a protestar

pero en fin a nosotros nos gustaría preguntarle si usted quiere decirle algo a la representante del partido popular y ciertamente la representante del partido popular está

mediática a una organización de estas características y la periodista de e i te be ante las protestas lógicas de la representante del pp le dice que no entiende que se enfade porque aquí damos voz a los dos

acción y también a la ciudadana que ha padecido esa acción absolutamente vergonzoso y explica muchos de los males que han venido ocurriendo en euskadi en las últimas décadas absolutamente impresentable la actuación de e i te be es absolutamente impresentable la actuación de esa periodista que sitúa en el mismo plano a una portavoz que está calificando como acción pacífica y legítima

a una entidad financiera con la ciudadana que efectivamente cumple con su obligación de llamar

y en fin pueden ustedes ver el video pero es que la periodista de e i te be le pregunta a la portavoz de ernai a quien se refiere cuando califica de

esas personas a las que está llamando la portavoz del pp para denunciar estos hechos y efectivamente la portavoz de ernai responde que

da por bueno o al menos no le corrige ni le dice absolutamente nada la presentadora de ese programa de e i te be en fin a nosotros esto nos parece

estamos de acuerdo con todo lo que ustedes han planteado estamos de acuerdo con la iniciativa original estamos de acuerdo con la transacción pero a mí yo quiero destacar

de un programa en concreto y de una presentadora en concreto por lo demás y en relación a la transaccional que finalmente se ha firmado y que nosotros votaremos

y la consolidación de la democracia posiblemente estemos de acuerdo los partidos políticos en que evidentemente cuando hablamos de espacios de encuentro nos referimos a la constitución española nos referimos al estatuto de gernika es decir nos referimos al estado y a la legalidad vigente cuando se reivindica por lo tanto espacios de encuentro nosotros lo que tenemos que decir es que esos espacios de encuentro ya los tenemos es el estado de derecho que nos permite o nos debería permitir disfrutar de todos los derechos ciudadanos

gracias señora presidenta señorías los socialistas vascos siempre hemos estado estamos y estaremos en contra de todos los actos de violencia callejera y los condenamos con firmeza condenamos todas las acciones de intimidación

siempre hemos estado y estaremos al lado apoyándoles a todas aquellas personas comerciantes empresas o entidades bancarias que como en este caso sufren las consecuencias de los actos de violencia callejera nosotros siempre hemos apoyado y hemos defendido que se aplique

una política de firmeza democrática y tolerancia cero para combatir con todos los instrumentos del estado de derecho a quienes practicaban la kale borroka organizada planificada y también aquellos que ejecutaban entiéndaseme entro comillas de forma espontánea violencia callejera

y que pusimos en marcha e impulsamos cuando estábamos en el gobierno que conseguimos que la violencia

desgraciadamente en los últimos tiempos todavía en algunas ocasiones como se ha relatado aquí surgen otra vez

parece que en nuestra sociedad todavía anidan comportamientos

nostálgicos de la violencia que quieren combatir la violencia pacífica

por la que los demás trabajamos todos los días por eso es muy importante que hoy todos

nuestra repulsa a estos comportamientos totalitarios que fijemos con claridad nuestro apoyo

estas acciones violentas y por eso es muy importante

una vez más los parlamentarios de eh bildu yo les emplazo a que muestren conjuntamente con todos nosotros el rechazo y la repulsa a estos

que digan con todos nosotros que este no es el camino es necesario que todos sumemos esfuerzos para dejar claro que

una sociedad sana ética y democráticamente decente no se puede practicar la violencia que tenemos que hacer el esfuerzo sí de recuperar a esta gente para la convivencia

pero tenemos que hacerlo juntos y yo emplazo especialmente a los parlamentarios de sortu para que sean coherentes y cumplan con lo que recogen sus estatutos que lo cumplan de verdad también con su voto porque ese será el mejor camino de construir el futuro en paz y en libertad todos juntos y de garantizar la convivencia pacífica basada en reglas que todos respetamos

a iniciativa del partido popular porque la compartíamos y por supuesto compartimos también

estamos de acuerdo como ya he dicho que el parlamento condene todos los actos de intimidación y de violencia callejera que se han producido y se produzcan en euskadi estamos de acuerdo

de intolerancia y violencia callejera que son conductas antidemocráticas que solo erosionan la convivencia democrática y estamos de acuerdo cómo no en prestarle todo nuestro apoyo a la ertzaintza para que siga desarrollando su labor y proteger con su trabajo

el estado de derecho cumpliendo con su obligación profesional por eso vamos a votar

agian quiero recordar que el motivo original de esta proposición no de ley aunque el debate haya girado por otro lugar era los incidentes registrados durante la jornada del uno de mayo esa era

que me corrija luego el proponente original por una mala traducción

que se nos envía a todos los parlamentarios y parlamentarias de esta cámara sin embargo hoy aquí en esta cámara hemos vuelto a asistir a un juego de confusión deliberado y premeditado

en la ponencia de autogobierno es nuevamente mostrarnos como una cámara anquilosada como una cámara que no mira a lasociedad y lo que es peor

que no es capaz de entender lo que pasa a su alrededor ayer justo ayer

que tuvieron que pasar dos años de cárcel en algunos casos fueron absueltos por la audiencia nacional

que además señaló que la incomunicación como la que hoy se le está practicando a otro ciudadano vasco

conlleva escenarios de impunidad y que en esos escenarios de impunidad la policía a la que parece que hoy hay que salvaguardar y proteger de una sociedad que parece estar en contra de ella

cuarenta jóvenes ayer acusados de pertenecer a eta todos los medios de comunicación así lo recogieron cuando fueron detenidos un veinticuatro de diciembre

han sido absueltos y sin embargo hoy de nuevo volvemos a las andadas hoy ponemos en el centro de mira a ernai

la claridad en la exposición otras veces son ellos quienes nos dicen que hablamos claro

él ha señalado cuál es el espíritu principal de esta iniciativa

en su intervención oral y la defensa de nuestros valores de hecho

bien es sabido en esta cámara que nosotros no compartimos esos valores que esos valores a los que alguien ha puesto apellidos ha desgranado nosotros no los compartimos por tanto

no ya solo de los señores de sortu en el grado de cumplimiento mayor o menos de esos estatutos sino del conjunto de eh bildu sea el de no secundar esta proposición no de ley como les decía por mucho que les genere sonrisas

unilateral y lo siento mucho que sea así y seguramente lo sentimos mucho ustedes

de los cristales de los escaparates rotos

de esa acción que no ha sido reivindicada por nadie ni siquiera por ernai

con los incidentes del tres de marzo que no los compartimos que no nos parecen las vías que hay que apostar por la lucha política y por la lucha democrática pero cuando lo que se pretende es

porque hay que decir las cosas como son las acciones de ernai a las que han hecho

personas que me han precedido en el uso de la palabra son acciones que consistían en arrojar pintura o en arrojar estiércol a entidades bancarias fundamentalmente

y en un momento en el que la audiencia nacional ha señalado que no se puede perseguir la acción política de cuarenta jóvenes ustedes

que parece que nada tienen que ver con el respeto a los cauces democráticos con el respeto a los caminos que esta sociedad tenga que emprender

que nosotros también compartimos pero como digo la causa y la decisión

se nos habla de la defensa del espacio público nosotros también compartimos que haya que defender el espacio público que haya que garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer uso del mismo no se nos ocurre mejor manera de garantizar eso que por ejemplo no limitando el derecho de manifestación y asociación como ha venido haciendo el partido popular cierto es que en algunas ocasiones con silencio conveniente de otros no se nos ocurre

que el de permitir que el espacio sea amable y acogedor para todos y no como hacen otras ciudades

no puedan ni siquiera recostarse o dormir en bancos ni en lugares esa es seguramente sus valores los que no compartimos ese es su modelo y nos hablaban también del carácter radical o antisistémico de las acciones que se venían a denunciar ya a estas alturas

si soy yo el antisistema si soy yo y quienes defendemos la ruptura con este régimen y la superación de este modelo capitalista generador de tantas desigualdades somos antisistema o son precisamente los antisistema

que se apropia de treinta millónes de euros y que con solo devolverlos no pisa un día de cárcel porque si la lógica es la inversa si el contrapoder y el relato o el contrarrelato es otro igual los antisistema son quienes defienden este tipo al conjunto de la ciudadanía quienes defienden que se atraque

no solo el presente sino el futuro de las gentes de este país y los que defendemos el sistema entendido este como un marco un modelo regulatorio de las relaciones interpersonales somos otros por eso les decía que no vamos a apoyar esta iniciativa

para poder hacer luego un buen debate a la que posteriormente le acompañaré espero con una buena réplica besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna

señora presidenta mire no hemos hecho este viaje para hablar de ernai

hemos traído una proposición que en la enmienda de transacción a la que usted ahora busca excusas para no apoyar no menciona para nada a

efectivamente en un cúmulo de acciones que se han repetido a lo largo de cuatro semanas hechos de los cuales unos cuantos han sido firmados por la organización a la que usted se refiere ernai

que es muy clara que dice que el parlamento vasco condena

semanas y muestra su solidaridad con las personas directamente afectadas oiga esto sirve para

y otros pero para los que se refiere a hechos violentos oiga si usted me dice que

que les señalen a usted el domicilio y que ataquen sus sedes oiga a mí lo de que ataquen mi sedes

democráticamente razonable claro que no compartimos los mismos valores estaría bueno lo que habría que preguntar es si ustedes tienen algunos valores cívicos y democráticos eso es lo que nos tendríamos que preguntar pero tenemos una proposición que

expresa una preocupación sobre los actos de intolerancia violencia callejera y conductas antidemocráticas que buscan erosionar nuestra convivencia no señala

que deberíamos compartir todos y que una cámara como la nuestra debería respaldar de manera unánime combatir las conductas antidemocráticas

la convivencia y dañar la democracia oiga no se busque usted excusas para no apoyar

mantener un compromiso con el fortalecimiento de la paz y la convivencia en euskadi oiga no busque excusas promover espacios de encuentro que favorezcan la consolidación de esa convivencia oiga pero usted qué me viene

nosotros estamos sometiendo aquí a votación un texto que debería si de verdad queremos trabajar juntos en defensa

no tiene la menor excusa para no apoyarlo y manifestar el apoyo y el reconocimiento a la ertzaintza en su labor decimos en su labor de proteger el libre ejercicio de los derechos

que creemos que si ustedes no lo apoyan es porque efectivamente carecen de la misma escala de valores que compartimos los demás

podrán ser legales pero desde luego su actitud no es decente ustedes podrán ser legales pero ustedes tendrán que demostrar que han hecho un recorrido democrático me preguntaba usted yo no sé si soy

no es antisistema usted es el sistema yo no sé la de años que llevo viéndole aquí usted sí sí usted forma parte del sistema usted es la cara del sistema

sabes cuál es el sistema la de que algunos se creen que este país es suyo la de

intimidando a los demás la de no respetar las ideas de los demás ese es el sistema instalado en nuestra comunidad el que nosotros hemos padecido

antisistema en euskadi militar en el partido popular revelarse contra la imposición del abertzalismo obligatorio eso es ser antisistema

en un instituto en una escuela o en una universidad es militar en el partido popular no ir a esos rebaños que ustedes manejan en los institutos en las escuelas y en las universidades para perpetuar el sistema ese sistema

y del que usted no se ha bajado cambia de siglas pero usted sigue en el sistema sí y si hace falta cambiar de valores los cambia

y se deja fagocitar por quien sea para seguir en el sistema pero usted no es revolucionario revolucionarios son los que dan la cara por la libertad cuando usted miraba para otro lado eso sí

mientras los demás sufríamos lo que usted llama tonterías estas de que le señalen a uno de que le tiren pintura de que le traten de intimidar o amenazar yo creo que usted no puede venir a darnos lecciones

que se puede ser legal pero desde luego cuando se carece de crédito democrático porque usted milita y comparte escaño con quienes en nuestra opinión carecen de crédito democrático yo creo que no puede dar

por supuesto que queremos agradecerle al señor maneiro su apoyo

en barakaldo su apoyo a la misma y también denunciar esos hechos producidos en aquel programa de e i te be es verdad que usted no ha presentado una enmienda

hubiesemos recogido y eso hubiesemos querido recoger efectivamente también la necesidad de involucrar como lo hemos dicho otras veces

a los medios de comunicación especialmente a los medios públicos en el combate contra los intolerantes en el combate contra aquellos que quieren permanentemente condicionar nuestra convivencia

presidente andrea señor matute ha intentado despistarnos yendo al texto original como

de una manera muy bíblica para huir y para no querer morder a lo que traemos a morder

a lo que es un pronunciamiento que yo creo que en cualquier otro momento de su

hubiera firmado sin ningún problema y hoy tiene que hacer usted aquí pues juegos malabares incluso

pie para un buen debate y nos promete brillante intervención

como casi todas las suyas señor matute estaría bueno después de tantos años en la tribuna del parlamento como si esto fuese un juego florentino y

estamos hablando de valores fundamentales en la construcción de una sociedad democrática el respeto al diferente el respeto a los bienes públicos y privados el respeto a los representantes políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía

que es del cuatro de junio antes de finalización del plazo enmiendas como es lógico habla

y violencia callejera que se han producido en euskadi en las últimas semanas y las que desgraciadamente continuaron produciéndose

ha querido hablar el partido nacionalista vasco con su enmienda y de eso habla también la enmienda transada con el grupo popular

eh bildu y no de todo lo demás entonces yo le pregunto cuando el parlamento vasco va a decir

con las personas directamente afectadas dónde está el problema para que eh bildu

o cuando dice que el parlamento vasco expresa su preocupación ante la existencia de actos de intolerancia

y conductas antidemocráticas que solo buscan erosionar la convivencia y dañar la democracia

promoviendo espacios de encuentro que favorezcan su consolidación que es algo que está defendiendo también eh bildu o algunos de sus representantes parlamentarios por lo menos

no están de acuerdo con la promoción de los valores de la paz y la convivencia no están de acuerdo con

en consolidar estos valores para euskadi mire yo no sé si

material para un buen debate o no lo que sé es que ha sido muy tramposo

y además es algo que usted yo creo que ha repetido también en momentos anteriores de su pasado político aquí ha habido durante años

no sé si mucha ni poca demasiada yo creo en cualquier caso que ha promovido una cultura de la imposición del insulto de la falta de respeto al adversario

concejal político ha habido

hacían ese tipo de acciones o peores a quienes asesinaban a quienes

y usted sabe que eso ha sido así y usted mismo creo que no sé si de manera directa pero si indirecta lo ha sufrido y lo ha denunciado durante muchos años cuál es el problema

en este momento qué ha cambiado por qué no ser capaces de dar un paso adelante y de decir que así no que ese no es el camino el camino para la consolidación de la paz y la normalización política

pasa por la asunción de un mínimo común denominador entre todos que es que el valor de la vida humana está por encima de cualquier idea política que el respeto

de la ciudadanía de los representantes políticos está por encima de cualquier idea y de eso se trata que no les gusta

en ese tercero pueden tener mayor problema para encontrarse pero en los dos anteriores en los dos anteriores solo veo cobardía y
ataduras a un pasado en el que les cuesta desembarazarse nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna mistoa upyd

gracias presidenta no sé si merece ya la pena volver a repetir los mismos argumentos

debates pero habrá que hacerlo y además va a quedar para la historia que tal día como hoy eh bildu una organización legalizada

decide no votar un texto perfectamente razonable y lógico

y creo que esto va a quedar ahí porque tal como otros representantes han señalado esta iniciativa dice lo que dice y por lo tanto eh bildu va a decidir otra vez hoy aquí pues no condenar los actos de intimidación y violencia callejera que se han producido en euskadi en las últimas semanas eh bildu va a decidir hoy aquí que no muestra su solidaridad con las personas

y va a quedar aquí que efectivamente eh bildu no quiere expresar su preocupación ante la existencia de actos de intolerancia de violencia callejera y de conductas antidemocráticas

la convivencia y dañar la democracia y que por lo tanto no se compromete

en euskadi promoviendo espacios de encuentro que favorezcan su consolidación

eh bildu con lo cual vuelve a demostrarse que puede ser una coalición de partidos políticos legal pero en absoluto democrático porque no es capaz de votar una transaccional de mínimos que lo que trata de defender es la democracia y el estado de derecho y la convivencia en euskadi y otra vez eh bildu se va a quedar sola

y tampoco va a manifestar su apoyo y reconocimiento a la ertzaintza en su labor de proteger

de los ciudadanos tampoco va a defender el estado de derecho y el mantenimiento de la seguridad pública esto es lo que va a decidir y va a decir eh bildu con su voto no hay mucho más que decir por lo tanto yo creo que sinceramente ustedes no tienen remedio son legales pero no son democráticos

hablan de represión cuando resulta que la portavoz de ernai se presenta porque le llaman de e i te be donde explica y justifica

esto es represión acaso ustedes hablan de cámara anquilosada por denunciar acciones de kale borroka cámara anquilosada y habla de bankia y habla de rato y habla de no sé quien más y habla de la troika no es esta cámara son los ciudadanos vascos

diga que no se puede seguir por esa vía y que por lo tanto hay que denunciar qué menos las acciones de kale borroka dice usted que se intenta criminalizar

claro es que para ustedes atacar sucursales bancarias y señalar a una ciudadana que decide avisar a la policía ante lo que está ocurriendo

remedio ustedes no tienen remedio evidentemente todos los demás

toda nuestra historia por los cauces políticos y democráticos por defender nuestras ideas con la voz y con la palabra por defender el estado de derecho la legalidad vigente todo esto es lo que nosotros defendemos es lo que usted llama nuestros valores

una cámara democrática condene los actos de violencia callejera y diga que hay que defender el estado de derecho y que apoye a su policía

pero en fin es que ustedes no lo entienden no lo quieren entender y yo creo que en definitiva no tienen remedio eskerrik asko maneiro jauna

la enmienda transaccional es fácil de leer no cita ningún grupo no habla solo

y por lo tanto toda su intervención es excusas para justificar la votación en todo caso

justifican la violencia justifican la violencia y he querido entender

que al menos en lo que hace referencia a algunas acciones

por esos malos comportamientos y si es así creame que lo lamento porque la violencia callejera sea planificada

nunca tiene justificación y usted que tiene derecho a cambiar debería ser coherente al menos con una parte de su trayectoria en esta cámara

planificada o espontánea para rechazarla y condenarla tiene derecho a cambiar pero en fin no sé si ahora

a estar más y compartir los planteamientos de podemos porque ha hecho referencia a una cosa de cámara referencia a esta cámara que no puedo compartir porque si esta cámara está anquilosada como usted ha dicho es la cámara de la que usted forma parte desde hace mucho tiempo

de la que usted sus compañeros de grupo como todos los demás

por prestar servicio al conjunto de la ciudadanía y por lo tanto debería ser más respetuoso con la cámara de que forma parte y si no ser coherente

que no las he visto en ningún momento para cambiar esa situación pero lo que es más importante mire la única posibilidad de que podamos ponernos de acuerdo

sobre una base muy sencilla la violencia no tiene justificación y solo se puede construir una sociedad ética y democráticamente decente una sociedad sana si se hace sobre este principio rechazando repudiando

violento creo que hoy una vez más ustedes

en la transacción que vamos a votar van a perder una magnifica oportunidad y una vez más el conjunto del grupo y especialmente los parlamentarios de sortu

eskerrik asko presidente andrea lo primero que voy a hacer es

tengo que decirle que no ha entendido bien y voy a ser persistente porque voy a decir lo mismo que dije

yo no he dicho que los destrozos en escaparates estén bien

vuelva a citar lo que cité en ese momento el papa francisco primero decía hace seis meses no hace mucho más hoy en muchas partes se reclamará mayor seguridad

pero hasta que no se revierta la exclusión y la desigualdad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos oprimidos pero sin igualdad de oportunidades las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión

el sistema a una parte de sí misma no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad esto nos sucede solamente porque la inequidad o la desigualdad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema sino porque el sistema social y económico es injusto de raíz por eso le decía señor oyarzabal que yo no sé quién es el sistema ni el antisistema de todas maneras no me esperaba

debate de ideas una batalla de ideas que se dice en cuba pero lo que me he encontrado

con respecto a mi trayectoria en esta cámara yo en la anterior legislatura no estuve en esta cámara por voluntad propia

otra gente no estuvo porque estuvo ilegalizada y ante eso ustedes como siempre

más allá de eso yo no he hablado de cámara anquilosada porque tenga temor a podemos quítense señores del partido socialista la preocupación con podemos o manténgala

a la estructura política en la que estamos esta cuando hablaba de su papel o contribución

en mi cabeza a podemos compartimos muchas de sus reflexiones y esperamos poder compartir muchas más en el futuro lo que no sé

de ustedes por centrarme en el tema ustedes hablan de los ataques a las

como si estos hubieran sido de napalm y yo creo que fueron de estiércol y de pintura

porque supongo que en eso no nos estaremos equivocando del todo luego ya sí nos hablan de rebaño nos hablan de las actitudes decentes yo no he mencionado de manera baladí a la troika o a la banca o caixa penedés o a rodrigo rato y lo de rodrigo rato lo he hecho de manera intencionada

porque claro es curioso que se nos hable de cuál es la actitud decente a sostener cuando se está si no mirando para otro lado siendo fiel esbirro de quienes están desahuciando a personas continuamente

ustedes no dicen nada ni en esta iniciativa ni otra y por eso nosotros no suscribimos estas iniciativas porque el día que nos traigan una posición completa multilateral que sea capaz de señalar la raíz

está provocando esta situación de fractura social probablemente nos verán porque la posición de eh bildu en esta cámara ha sido es y será clara con respecto a la violencia no compartimos la acción violenta venga de donde venga no estamos de acuerdo con otra vía que no sea la pacífica política y democrática pero de ahí a bailara su son

quiere recorrer con ustedes eso es lo que tendría que hacerles reflexionar y por lo que les decía que quizás a lo mejor están perdiendo un poco de perspectiva porque su posición y este es el debate que yo quería mantener es una posición altamente peligrosa yo he aguantado

que parafrasear a gustavo adolfo bécquer cuando decía tú me preguntas qué es la poesía la poesíaeres tú sustituya poesía por fascismo y dese por respondido y respecto

lo que ustedes quieren hacer aquí es hacer de la propuesta delito y de la protesta delito es decir criminalizando la protesta eliminando la disidencia eliminar la propuesta política esa doctrina la utilizaron hace tiempo para lo que tiene que ver con el llamado contencioso vasco en esta tribuna no solo yo

ante una kale borroka que nadie parece que vive tan intensamente como ustedes quieren volverlo hacer probablemente la próxima vez puedan traer a modo preventivo como se hacen ahora las cosas una sentencia condenatoria sobre cualquier masacre que pueda haber en kuala lumpur o en ulán bator o en donde sea lo votamos aunque no haya sucedido y si eh bildu no quiere votarlo podremos acusarla y tildarla

donde no existe para tapar la verdadera inseguridad que generan quienes están provocando la fractura social que estamos sufriendo y viviendo cada vez más decenas de miles de personas

sí muchas gracias presidenta esta es una iniciativa que pretende al menos ser un paso un primer paso al menos

eliminar el aforamiento españa no necesita más aforados sino menos en concreto ninguno no debería haber

ni en españa y esto es lo que nosotros defendemos con nuestra iniciativa tengo que decir que

no ha sido posible llegar a ninguna transaccional con el grupo socialista quizás

de lo que diga la señora gallastegui pudiéramos llegar a firmar algún tipo de transaccional que pusiera de manifiesto que este parlamento o al menos

no está de acuerdo con que existan tantos miles de aforados en españa y que por lo tanto deben darse los pasos necesarios para acabar

ya veremos si esto es posible porque ciertamente y en concreto en la asamblea de madrid fue posible no hace demasiado tiempo que una iniciativa relacionada con el aforamiento saliera aprobada con el voto de upyd del partido socialistas y de izquierda unida

como consecuencia de la mayoría absoluta del partido popular pero parece ser que

el partido socialista está dispuesto a recorrer ese camino veremos en que queda en todo caso el debate de hoy la inviolabilidad

en el ejercicio de sus funciones y la inmunidad somete determinados procesos al requisito de la autorización legislativa respectiva evidentemente esto a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días no hay que confundirlo con el aforamiento

en beneficio de determinadas personas quienes tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados las indicadas prorrogativas parlamentarias fueron ciertamente asumidas por la constitución

que las contempla en su artículo setenta y uno en el marco de un estado que se define como social y democrático de derecho en nuestra opinión no tienen cabida

el aforamiento pudo tener sentido en el pasado pero hoy en día como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y asociaciones judiciales supone

se ha pretendido justificar alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos movidos por razones políticas pero la verdad es que tal argumento resulta incomprensible en el día en un estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentalización política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia

la independencia de los jueces y de los tribunales la figura del aforamiento ha sobrepasado ampliamente el propio

de designación política y a toda una pléyade de cargos públicos la institución del aforamiento ha sufrido una expansión en los últimos años el aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales

previsto por la ley por ejemplo según el artículo setenta y uno punto tres de la constitución española en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal

y sus ministros el aforamiento supone una excepción al principio una diferenciación una distinción de trato porque precisamente los altos tribunales del estado como el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia son los más susceptibles de politización habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados interviene directamente el consejo general del poder judicial a cuyos miembros nombran a su vez los partidos políticos mediante un calculado sistema de reparto de cuotas además

deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente perdiendo así el caso la figura del aforamiento

y provoca disfunciones y algo que nos parece ciertamente importante en los tiempos que corren una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia

para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural también por ello hay que suprimir

aforados y es que en nuestro país no solo están aforados los parlamentarios y senadores

han hecho lo propio distintas comunidades autónomas extendiendo dicho privilegio a los parlamentarios autonómicos

y miembros del gobierno regional en fin los vocales del poder judicial los magistrados del tribunal supremo y de la audiencia nacional el presidente del tribunal superior de justicia los fiscales de sala del tribunal supremo y de la audiencia nacional

los adjuntos al defensor del pueblo por cierto nuestro ararteko recientemente calificaba de vergüenza el mantenimiento del aforamiento hace apenas unos días

los generales del ejército los almirantes el fiscal togado los defensores del pueblo autonómicos y los miembros de la policía nacional guardia civil policía autonómica y hasta la policía local unos aforados al tribunal supremo otros a los tribunales superiores de justicia

idéntico anacrónico privilegio los más perjudicados los más perjudiciales son aquellos que afectan a los cargos de designación política porque se percibe por la ciudadanía y esto insisto es muy importante como un privilegio creado a fin de proteger a tales cargos de posibles imputaciones por corrupción política aumentando la sensación de impunidad de la clase política

de la ciudadanía portugal e italia no tienen más que un

de la república francia tiene entorno a diez aforados en alemania no hay ningún aforado en reino unido no hay ningún aforado

aforado en fin de ahí nuestra propuesta original instar al gobierno vasco instar al gobierno de españa a dar los pasos que sean necesarios para suprimir el aforamiento nosotros estábamos dispuestos seguimos estando dispuestos a quizás poder llegar a algún tipo de acuerdo con el partido socialista para dar

al menos en esa dirección que los ciudadanos perciban que los partidos políticos queremos cambiar algunas de las cosas que

les preocupa por lo tanto razones por las cuales queremos suprimir el aforamiento todos los ciudadanos deben ser iguales

el mismo trato el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad una diferenciación y una distinción de trato a los aforados les juzga el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia en lugar de los tribunales ordinarios el aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y una sensación de que la justicia no es igual para todos a los aforados se nos trata de modo distinto que al resto de los ciudadanos razón suficiente para dar los pasos necesarios

institución se trata por lo tanto de defender la igualdad se trata por lo tanto de acabar con los privilegios de acabar con los blindajes

se trata de regenerar la democracia se trata de recuperar la confianza de los ciudadanos de estar en definitiva a la altura de lo que se nos

no necesita más aforados sino que necesita menos en concreto ninguno no debería haber ningún aforado todos deberíamos ser